presidenta como la señora presidenta nos ha explicado hoy vamos a votar el dictamen de los presupuestos de la ley de presupuestos para el año que viene del gobierno vasco que es un dictamen que evidentemente es mejor

que el grupo popular planteó al inicio de la tramitación de este presupuesto enmiendas que recogen las prioridades que este grupo ha planteado desde el principio de la legislatura incluso la legislatura pasada como es el empleo

los centros especiales de empleo la economía social las familias las familias con hijos la conciliación de la vida familiar y laboral

retuerto las ambulancias la farmacia hospitalaria el apoyo a las asociaciones

en justicia incrementar la justicia gratuita o que se puedan hacer en los palacios de justicia espacios de atención a las víctimas de violencia de género y a sus hijos en educación la apuesta por la fp especialmente la dual los conciertos

o incrementar el departamento de comercio y turismo en más del seis por ciento de la previsión inicial o en infraestructuras con las líneas cuatro y cinco del metro

para favorecer los equipos femeninos de baloncesto de élite o de balonmano y cooperación al desarrollo que son digamos las prioridades que este grupo ha manifestado y ha tenido siempre pero es evidente que no es por estas enmiendas por lo que nosotros

dos mil dieciocho que viene tengamos presupuestos nosotros hemos llegado al acuerdo con el gobierno por estas cosas sí pero básicamente por el acuerdo fiscal al que llegamos con la fiscalidad que afecta a las empresas

en la creación de empleo y en el mantenimiento del empleo y nosotros entendemos que es bueno que haya estabilidad y creo que se está demostrando en este año por ejemplo

el crecimiento económico el crecimiento del empleo pero también tenemos que decir que no es nuestro presupuesto

primero que el gasto corriente se incremente de la forma que se incrementa cada año sin apenas control no es normal

en estos últimos años que no haya hecho un autoexamen de conciencia del entramado institucional que tiene de cuánto es útil y cuánto no es útil

no estamos de acuerdo con cómo se financia o sobrefinancia el euskera o la etb o

funcionan por ahí y no sabemos exactamente para qué señor lehendakari que incluso

lo que se paga a determinados altos cargos que pululan por esos sitios en cualquier caso es evidente que la estabilidad política

hay que aprovecharla para hacer las reformas que necesita este país y nosotros se lo venimos demandando desde hace tiempo nosotros

que necesitan reformarse uno es el tema de familia yo no voy a volver a repetir aquí la pirámide

y es evidente que tendremos que reformar el sistema de ayudas a las familias con hijos el sistema de ayudas sociales

y por lo tanto esa reforma tiene que venir junto con la otra cuanto antes mejor y evidentemente intentar llegar al máximo de acuerdos y hay otra gran pata que nos está fallando mucho que es la educación es la educación y no porque gastemos poco como dicen algunos

sino porque no parece que esté dando los resultados que todos desearíamos y no los está dando en los resultados de pisa no los está dando en resultados de comprensión

y es evidente que todo esto hay que reformarlo y que algunas prioridades con el euskera en educación que se han tenido durante tantos años

en las escuelas en educación y nosotros vemos señor lehendakari cierta falta de rumbo en determinadas cosas

cierta falta de rumbo como la hemos visto en la reforma fiscal que cada uno decía una cosa y al final

pero vemos cierta falta de rumbo en temas que son muy importantes para nosotros

paz y convivencia no entendemos qué está haciendo el gobierno vasco

tres importantes de dos de ellos ya he hablado paz y convivencia con informes que deslegitiman la propia actuación del gobierno vasco no lo entendemos nosotros no lo entendemos el señor lehendakari

no lo entendemos en absoluto no entendemos a dónde se quiere ir no entendemos por qué se quiere dar argumentos de dos bandos que nunca existieron porque así no vamos a llegar a ningún sitio no entendemos la equiparación perpetua de cada vez más víctimas distintas

y no creemos que aporte nada y hay otro tema que es muy importante que es el tema del autogobierno

tenemos una ponencia tenemos una ponencia en la que llevamos ya cinco años de ponencia

y una ponencia en la que la estabilidad en el país está muy bien pero la estabilidad sola no es suficiente para que las cosas vayan bien y lo estamos viendo y lo hemos visto en cataluña

ni mucho menos porque las empresas los inversores

lo que quieren también es seguridades jurídicas y seguridades de planteamiento y claro la falta de rumbo o de criterio no es lo mismo que en esa reforma del estatuto se haga una reforma del estatuto o se esté planteando otra cosa no es lo mismo

que haya que incorporar o no haya que incorporar el derecho a la independencia porque no es lo mismo porque usted sabe y nosotros sabemos que la estabilidad está muy bien pero eso desestabiliza todavía mucho más

pensamos que ya no estamos en el ecuador de la legislatura pero casi vamos a empezar el ecuador de la legislatura y es evidente que los vascos necesitamos certezas de a dónde se quiere ir nosotros hemos marcado nuestras prioridades hemos marcado nuestras prioridades se las hemos marcado en el presupuesto de este año

le hemos dicho cuáles son son las familias son el sistema de ayudas es la educación y es la reforma de la administración

y ahí nos van a encontrar para llegar a acuerdos para hacer esas reformas hombre para hacerlas en el sentido correcto

no para hacer cualquier reforma no se trata de reformar por reformar se trata de reformar la educación para que sea mejor se trata de reformar

en la finalidad que pretenden se cumpla mejor y se trata de reformar las ayudas sociales para lo mismo para que la finalidad que tienen llegue mejor y no estamos hablando de recortar nada probablemente estamos hablando de incrementar los gastos pero evidentemente

no está funcionando bien y si no funciona bien ahora que tenemos una época de estabilidad que tenemos una época de crecimiento ahora que empezamos a tener más recursos pues parece que lo conveniente y lo pertinente sería que este gobierno empiece a tomar nota y empiece a liderar estar reformas que son necesarias para todos los vascos pero como país

iremos languideciendo poco a poco poco a poco eso sí con muchos jubilados y muchos pensionistas con las pensiones más altas

los jóvenes que viven y trabajan aquí los jóvenes preparados no preparadísimos pero que están trabajando fuera y este gobierno tiene un plan para traer esos jóvenes yo vi los resultados en los dos últimos años han venido dos dos

pues es evidente que ese plan no está funcionando tampoco es decir hay que reformar hay que reformar muchas cosas para mejorar no le estamos estamos diciendo le estamos poniendo deberes señor lehendakari para el año que viene

nuevo pero pero evidentemente le tenemos que poner deberes porque nosotros queremos que al país vasco le vaya bien no que le vaya mucho mejor

que crezcamos porque nuestros jóvenes pueden trabajar en el país vasco porque en el país vasco se crean puestos de trabajo de los buenos de las empresas buenas de los industriales

gente y hasta la fecha eso no lo estamos consiguiendo y por eso nosotros señor lehendakari le volvemos a mostrar cuáles son nuestras prioridades le décimos en qué no estamos de acuerdo con lo que está haciendo su gobierno y le volvemos a tender la mano para ponernos de acuerdo

estos problemas que creemos que son los importantes para los vascos eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak

guztioi aun a pesar de que otros esperaban otra expresión

guztioi el grupo socialista afronta este último debate del año con la convicción de que dos mil diecisiete ha sido más fructífero para la ciudadanía de lo que algunos van a pretender trasladar incluso en esta misma sesión

por segunda vez en ocho meses a unos presupuestos porque hayamos sido capaces de generar las condiciones para lograr ese apoyo sino porque esas cuentas

con absolutamente todos y cada uno de los grupos que la componen

un gobierno en minoría capaz de ir tejiendo alianzas y de ir incorporando a su programa las mejoras que se le ofrecen desde la oposición

de fondo y no hay que irse muy atrás para que todos seamos conscientes de que las cosas podrían haber sido distintas el primer año de la pasada legislatura pasó en blanco

en esta hemos aprovechado desde el minuto cero con un programa tasado sectorialmente con objetivos bien definidos con un planteamiento abierto al pacto con todos

adelante y con todas las propuestas de reforma encarriladas con el aval de amplias mayorías en el parlamento hoy lo que vamos a hacer es contar con una herramienta los presupuestos se traducen para el próximo año en euros todos nuestros compromisos políticos

y los pactados en este año con la oposición hoy vamos a aprobar unas cuentas que van a reforzar nuestra sanidad pública que aumentarán

que permitirán seguir facilitando que cada vez menos familias dependan de esas prestaciones porque encuentran oportunidades

que se extenderá el derecho a la vivienda que se atenderán a más colectivos con pocos recursos que no pueden pagar

perdón de luz y de gas unas cuentas que abren las puertas al empleo público y estable

esto esto que les digo es lo que está en la ley que hoy vamos a aprobar

pero sí pondrán soluciones para que el año que viene por estas fechas hablemos de menos paro de más cotizantes de menos precariedad y de más igualdad

debe saber que estamos en un camino que por parte de los socialistas no va a tener marcha atrás por eso lamentamos lo que ha pasado en la tramitación de estas cuentas entendíamos aunque no compartíamos que el precedente de abril seguramente respondía a un postureo por parte de algunos grupos de situarse

parlamentario pero si cada semana en plenos y comisiones vamos tejiendo complicidades y consiguiendo acuerdos bien por unanimidad hasta en la cuarta parte de los asuntos que debatimos o en otras tantas alcanzamos acuerdos con eh bildu y podemos con una cuarta parte con el partido popular

si lo encauzábamos presupuestariamente nos abría la puerta a contar con la misma voluntad amplia de acuerdo

con todos pero no ha sido así se han cruzado cosas ajenas a la lógica y al interés ciudadano ofrecimos las cuentas a los tres grupos de la oposición

eh bildu decidió desde el principio no acordar porque lo que pretendía no era aportar en positivo sino presentar una moción de censura encubierta al actual gobierno y expulsarnos

pues no podía comprometer ningún acuerdo y el partido popular oportunidad para influir puso sobre la mesa ciento treinta enmiendas para reforzar cuestiones que ellos consideraban necesarias y esto es lo que da la capacidad de pactar capacidad para influir algo que todavía algún grupo no ha interiorizado aunque no es menos cierto que cada uno decida hacer con los escaños que le ha confiado la ciudadanía

oportuno la realidad es que hoy viernes veintidós de diciembre de dos mil diecisiete es que al igual que con los presupuestos de dos mil diecisiete no se nos ha ofrecido ninguna propuesta alternativa

se ha reproducido tanto por eh bildu como por elkarrekin podemos el mismo patrón o casi el mismo esquema que realizaron hace ahora siete meses

y con los mismos potentes y desarrollados fundamentos se puede gestionar mejor gasto excesivo no se adecua a los parámetros de dos mil trece y en el mismo sentido

de qué sirve que se les explique por activa y por pasiva y como diría una amiga mía ayer por la noche por perifrástica

del tav ni son reales ni son factibles que sabemos que las usan solamente para poder maquillar los totales que dicen movilizar con sus propuestas porque sabemos que entienden que ustedes comprenden cuando se les dice que son ingresos finalistas pero claro

que si no se presenta lo del tav pues la cosa en cuestión de cifras y para la prensa pues queda escasita como para poder decir que ustedes tienen una alternativa al modelo

vasco hoy defenderán como pasó también en los anteriores presupuestos muchas menos enmiendas de las que inicialmente presentaron

unas pocas enmiendas que dicho con respeto nos parecen testimonialistas enmiendas necesarias para que ustedes puedan construir hoy

ni tan siquiera traen la financiación para ellas se han preocupado del gasto del gasto que les permita construir hoy el discurso y tan si quiera de donde lo financiamos

como este grupo pasó de puntillas por la comisión de economía y no se molestó tan siquiera en defender sus propuestas pues esperaré a escucharles en su turno

en contra de esos dos coma siete millónes de euros que ustedes se empeñan en que destinemos a una consulta a la catalana

créannos que nosotros se nos sentimos orgullosos de saber que estamos en un gobierno que no va a hacer cosas ilegales y que es un auténtico orgullo poder decirle a la ciudadanía que no nos vamos a despeñar por el caos que se ha provocado con

sus socios catalanes ambos grupos

o en sanidad lo que nos sigue llamando la atención es la gran diferencia en la que unos y otros cuantifican determinadas condiciones de dignidad

exactamente en el mismo importe en que lo harán los salarios de los empleados públicos ustedes reclaman más

discurso rotundo pero como les hemos dicho también más de una vez les conviene mirarse allí donde gobierna en navarra por ejemplo para después decir

en otros lados con respecto a los planes para zonas comarcales es verdad que es una preocupación que compartimos con los dos grupos de la oposición que hoy proyectan determinadas cuantías pero deberán reconocer que estos presupuestos cuentan con recursos para las actuaciones a desarrollar en las comarcas que ustedes mencionan y convendrán también conmigo que deben ser receptivos a la asignación de recursos que se está realizando también desde otras instituciones para intervenir comarcas me estoy refiriendo al acuerdo que se ha logrado recientemente para el enkarterri

los planes que se han puesto en marcha de la diputación alavesa para la comarca de ayala y también deberán ser receptivos a lo que en poquito tiempo seamos capaces de acordar entre nosotros para la margen izquierda y la zona minera y habría que recordarles que aquí

ha presentado una propuesta para decirnos que hay que realizar un plan de choque que cuando este plan de choque tenga detectada las necesidades hará un calendario y cuando tenga ese calendario hará las aplicaciones presupuestarias oportunas con lo cual es difícil entender por qué

en la que no se ha podido trabajar todavía dejo aquí estas cuestiones que se refieren a las enmiendas reservadas y paso ahora a otra cuestión en este trámite a diferencia del que pasamos a primeros de año para aprobar las cuentas del diecisiete en aquel

que otros habían realizado aunque no coincidieran exactamente con las suyas este año en cambio ha habido precisamente eso un cambio de estrategia

y menos acomplejado que eh bildu en la defensa y votación de las diferentes enmiendas en la comisión de economía y creo que saben por qué lo digo

sus enmiendas y el apoyo la abstención o el voto en contra de las propuestas del partido popular y ha apoyado o se ha abstenido en un buen número de ellas noventa en concreto eh bildu en cambio ha optado por la mayor porque eh bildu se ha sentido acomplejado durante muchos meses de compartir

probablemente será para que no se lo recordemos para que no le recordemos que otros han sabido introducir mejoras que comparte y que ellos no son capaces de dar ese paso que han optado en este momento por votar en bloque a todas daba igual que fuera para incrementar los fondos de cooperación que los de euskaltzaindia

y no qué propone han retornado a la mala costumbre que ya tenían la pasada legislatura cuando nos rechazaban todas las enmiendas que incluíamos nosotros para luchar por ejemplo contra la pobreza energética

que se llevaba en pacto presupuestario así que vuelta a la vieja táctica aunque con el cambio se les pueda tachar de incoherentes la orden fue rápida y tajante

si lo presenta el pp se vota en contra aunque sea la misma enmienda que se presentó el año pasado y la que votamos a favor

o una enmienda que responda dotar de mayor financiación a acuerdos que después bajan a esta cámara

y toman como bandera y defienden en el debate parlamentario con mucho ardor

había que votar que no si es del pp no y no en cambio reconocemos que elkarrekin podemos ha medido un poco más

pero en conjunto y aunque no compartimos muchos de sus argumentos y posiciones sí es verdad que creemos que ha sido algo más coherente con su posición en cualquier caso no voy a presumir lo que este grupo diga en cuanto yo acabe

no me voy a adelantar esperaré al segundo turno aunque sí les quiero decir una cuestión y es que a los socialistas nos pueden diferenciar por algo

nosotros no estamos en este parlamento ni en ninguna otra institución ni para marcar a nadie

y sabe por qué porque nosotros tenemos algo más importante que hacer con nuestros escaños con los escaños que nos confía la ciudadanía y es influir en las políticas para que haya oportunidades de empleo

en el paro y menos familias que dependan de ayudas o prestaciones para que ofrezcamos oportunidades de empleo público que refuercen nuestros servicios en sanidad y en educación y esto es lo que volveremos a hacer hoy aprobando estos presupuestos

noticia la aprobación del instrumento económico fundamental para el gobierno y creemos que será mejor si conseguimos el que para nosotros va a seguir siendo nuestro empeño durante

todos ustedes en las reformas que tenemos por delante y que seamos capaces de decir que fuimos partícipes de una legislatura en la que se logró un mayor avance social
y unas mayores oportunidades para todos y todas eskerrik asko eskerrik asko

egun on denoi bien en nuestro caso si el proyecto de presupuestos inicial no nos gustaba

aún menos los presupuestos que se aprueban hoy gracias al entente pnv

original de hecho si atendemos exclusivamente a las modificaciones presupuestarias aprobadas en el debate de enmiendas parciales podría parecer que el partido popular

estos presupuestos pero esto no es así el precio que han tenido que pagar ustedes al partido popular ha sido un precio alto aunque la moneda de cambio no haya sido una modificación sustancial del presupuesto y menos aún de sus prioridades

creemos que ha sido un precio alto para el partido socialista han aceptado ustedes una reforma fiscal regresiva netamente de derechas y profundamente

y que rechazaban los sindicatos la reforma fiscal que beneficia al capital y perjudica a la mayoría de este país para sacar adelante estos presupuestos han tenido que aceptar una vieja aspiración de la derecha la aplicación de una política fiscal que reduzca

aumentar en definitiva la diferencia de lo que pagan las rentas del capital respecto a lo que pagan las y los trabajadores estamos hablando por lo tanto que van a aprobar estos presupuestos a cambio de arrodillarse solo ante los que más ganan

lo décimos porque estamos convencidos de que no están de acuerdo con esa reforma fiscal

y ustedes han aceptado pagar el precio para poder mantenerse

esto es legítimo no diremos nosotros que no es legítimo cada cual efectivamente toma sus decisiones y como se suele decir que cada palo aguante su vela

para una buena reforma fiscal desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza y la justicia social no quieran hacernos comulgar con ruedas de molino no estamos ante unos presupuestos pactados a cambio de una reforma fiscal

un modelo presupuestario con el que el partido popular se siente cómodo por eso ha puesto el peso de la negociación en la política fiscal y no en los propios presupuestos y finalmente el partido popular ha conseguido la pieza que perseguía

hubiera rechazado este intercambio reforma fiscal del partido popular a cambio de aprobación de los presupuestos del pnv ha supuesto además

enmiendas centradas en el empleo la igualdad de género y los servicios públicos este intercambio ha supuesto el rechazo en bloque

de nuestras enmiendas para impulsar las comarcas más desfavorecidas de euskadi unas enmiendas pensadas para aquellas zonas que necesitan en estos momentos una atención especial para ello proponíamos planes de choques con cantidades importantes para zonas como oarsoaldea meatzaldea ezkerraldea y encartaciones

partido popular y todo esto ha sido posible porque estamos viendo cada vez

que el modelo de este gobierno está cercano al modelo del partido popular y por lo tanto nos preguntamos también hoy si como ya pasará hace un año

será el que permitirá en un futuro cercano también a mariano rajoy sacar adelante los presupuestos generales del estado cuestión que nos preocupa pero en definitiva

han pagado al partido popular para sacarlos adelante una reforma fiscal de derechas

suposatzen du hau da alderdi popularraren ikuspegi fiskalaren zati garrantzitsu bat babestea nosotros desde luego no estamos de acuerdo con ello y votaremos

alderdi popularra izan da bulegoetan sinatu den akordio honen irabazle nagusia porque hoy el partido popular impone sus políticas antisociales en euskadi y lo hace porque el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi quieren el partido nacionalista vasco quiere porque así se amarra bien amarrado al poder el pse realmente no es que quiera pero es que no lo queda otra más que seguir diluyéndose

decía esta semana la señora mendia y lo decía sin sonrojarse que el pse hace políticas de izquierda que se lo pregunten a la señora castelo cuando firmaba la rebaja fiscal a la patronal si estaba haciendo políticas de izquierda o no y señora castelo

es que ustedes pacten reiteradamente con la derecha sin embargo todo esto no son simples juegos de partidos son la constatación de la falta de interés de esos tres partidos en

que no sale del paro o que ve que su empleo no mejora que vive en comarcas como la margen izquierda el bajo deba aiaraldea o enkarterri en las que todos los meses cierra o entra en crisis alguna empresa industrial o que se lo pregunten a las mujeres de este país que ven

necesarios y esta es la realidad a la que no miran sus presupuestos

a precio de oro para el señor azpiazu pero no hay dinero para mejorar el empleo

lo que les falta de decencia a la hora de pactar con el partido popular y hoy en esta cámara se van a aprobar unos presupuestos que no pueden entenderse sin hablar de fiscalidad y hay que hablar de fiscalidad aunque a algunos les duela ya que es incomprensible que el pnv haya entregado la política fiscal de euskadi al partido popular

de la ciudadanía vasca el pnv ha pactado con el pp justo lo contrario a lo que venía reclamando el propio consejero de economía del gobierno vasco durante todo este año

no se hubiera dado si el partido socialista de euskadi hubiera querido porque la realidad es que hoy en esta cámara dan los números y es necesario que en el territorio haya estructuras económicas y sociales modernas y cohesionadas personas formadas y menos desigualdad

y no para rebajar a la patronal para lo que sirve una buena política fiscal ustedes los que en marzo decían que no que de ningún modo podía negociarse un presupuesto junto a la política fiscal lo hacen hoy cuando lo impone el partido popular dónde está su palabra

se lo digo yo está en el mismo sitio que cuando hablaba de reformas fiscales integrales o de subir la presión fiscal a las grandes empresas pero que nadie

y es que estos tejemanejes solo son posibles porque el pse quiere

si el pse hoy quisiera la patronal pagaría los impuestos que debe

los rentistas no pagarían hoy en día menos impuestos que los trabajadores y las trabajadoras vascas y hoy la pregunta es si el pse quiere si de verdad el pse va a dar más valor a sus acuerdos con la derecha que a lograr una política fiscal justa en este parlamento

desde esta misma cámara a la señora mendia y a la señora castelo si el pse está dispuesto a llegar a un acuerdo fiscal con las fuerzas progresistas para acabar con esta injusta política fiscal y como era de esperar callaron y es que el pse lleva muchos meses callando

y como dice el refrán el que calla otorga y gracias a ese pacto hoy se van a aprobar unos presupuestos que no generan confianza en la mayoría de vascos y vascas progresistas

es igual al modelo económico del partido popular unos presupuestos que importan a euskadi las políticas fiscales del partido popular sus políticas de austeridad y sus recortes encubiertos sus tratos de favor a determinados colectivos el abandono de los servicios públicos

hemos realizado más de cuatrocientos cincuenta enmiendas parciales con un valor superior a los doscientos veinticinco millónes de euros

en primer lugar nuestra apuesta por la creación de empleo de calidad

algo que sinceramente con la que está cayendo es urgente en segundo lugar impulsar el desarrollo económico de las comarcas más castigadas por la crisis industrial y por el desempleo tratar de poner freno a esa euskadi de dos velocidades

en tercer lugar transversalizar las políticas de igualdad en todos los departamentos del gobierno

ante el evidente repunte en euskadi cuarto apoyar el sistema educativo público apostando por su calidad y dotándolo de una financiación suficiente y adecuada invirtiendo en la mejora y en la construcción de nuevos centros y en quinto lugar

y que reviertan los recortes realizados en los últimos años entre otros los tijeretazos del señor patxi lópez miren

comparemos prioridades fíjense que nuestras prioridades son las que hubiera firmado cualquier ciudadano o ciudadana vasca comparemos comparemos las nuestras

que ustedes van a aprobar hoy empecemos por el empleo y la política

empleos se marca el pnv el objetivo de recuperar el nivel de empleo previo a la crisis

y esto no es que lo diga yo es que lo dicen sus cuentas y lo dicen ustedes mismos sabe el pnv decir a la ciudadanía cuál va a ser el impacto que estima en creación de empleo de estos presupuestos

callaron callaron porque no tenían ni idea del impacto que este presupuesto tendrá sobre el empleo en nuestro país pero hoy vamos a volvérselo a preguntar

nuevos de los que ustedes hablan qué parte tiene que ver con el ciclo económico con el viento de cola al que en reiteradas ocasiones

tienen ustedes en cuenta en sus previsiones que hay una doble tendencia a la destrucción de empleo y a la creación de empleo de poca calidad empleo precario de qué tipo es el empleo que se va a recuperar respecto al destruido

van a ser fijos y cuántos temporales cuántos van a ser a jornada parcial cuántos van a tener duraciones inferiores a los tres meses porque visto el peso del presupuesto en la economía vasca es muy poco claro

y la realidad es que ustedes no quieren asumir como objetivo recuperar el empleo perdido ustedes

eso sí cuando los pagamos el resto a precio de oro mucho marketing

pero ni un euro de apoyo a la naval a cel y a unipapel

seguro que la señora tapia siempre

se entera de estos cierres y empresas en crisis a través

no hace falta que finja indignación con el próximo cierre de una empresa industrial que le coja por sorpresa bien yo quiero que me expliquen hoy una cosa a ustedes

presumir y presumir de su gestión de sus acuerdos de sus pactos con el partido popular de que tengamos el mejor presupuesto de toda la historia

pero quiero que de verdad me expliquen por qué esta financiación esta lluvia de cientos de millónes que pronostican no llegan a las políticas de todo ciudadano y de toda ciudadana vasca por qué no hay dinero para el empleo por qué no hay dinero para la inspección de trabajo

han muerto treinta y uno trabajadores en sus puestos de trabajo pero ustedes siguen sin poner los recursos necesarios en la inspección laboral

lo dice el director de osalan estas muertes

y es una cuestión de recursos recursos que este gobierno no pone porque este gobierno no tiene entre sus prioridades la siniestralidad laboral de verdad creen señora mendia y señora castelo

hoy se van a votar enmiendas de elkarrekin podemos para dotar de recursos a la inspección de trabajo dos millónes exactamente

van a oponerse pnv pse y pp la lluvia de millónes del cupo

tampoco llega a las comarcas que peor lo están pasando hemos propuesto asegurar la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía vasca a través del diseño de políticas de desarrollo territorial

sería treinta y cinco millónes de euros y ustedes una vez más han dicho que no han dicho no a crear un plan de choque en la zona minera han dicho no

en enkanterriak han dicho que no a crear un plan de choque en la margen izquierda en oarsoaldea o en araialdea y ustedes han dicho que no

tienen relación directa con los índices de paro con la dotación de equipamientos e infraestructuras

y la ciudadanía vasca debe saber que ustedes han dicho que no a revertir esas situaciones pero no nos quedamos ahí también hemos propuesto un plan de empleo

a crear el plan de empleo enplegua martxan destinado a la creación de puestos de trabajo para personas que tengan agotado a prestación por desempleo por un valor de treinta y dos millónes de euros un plan para luchar contra ese noventa y cinco por ciento de temporalidad contra ese sesenta por ciento de jornadas parciales

una vez más han dicho que no y les hemos propuesto la creación de un fondo de capital riesgo para la entrada en el capital de sociedades industriales que se encuentran en dificultades por valor de veinte millónes de euros

y les hemos propuesto reorientar la errática política de desarrollo económico de su departamento hemos hecho enmiendas por valor de más de cien millónes de euros y ustedes saben que han dicho

ustedes han dicho que no y con estas respuestas

precariedad o la situación cada vez más crítica de diferentes comarcas de euskadi

por el pnv en forma de lluvia de millónes del cupo tampoco ha llegado a las políticas de igualdad miren sí que en elkarrekin podemos hemos propuesto ambiciosas en materia de igualdad y lucha contra las violencias machistas pero es que lo suyo es algo más que cicatero es mísero

la señora gorospe intentó explicarnos con un sermón vacio todo lo que su gobierno hacía en esta materia pero aparte de las incoherencias flagrantes en que incurrió no supo explicar cómo era posible que este año tengan previsto gastar menos en igual que el año pasado uno millón de euros exactamente menos

esto es lo que hace el pnv mucho ruido y pocas nueces mucha inauguración mucho eslogan pero poco recursos reales para luchar contra la desigualdad entre mujeres y hombres pocos recursos para acabar con las violencias machistas

de presupuestos de la que se jactan destinan aún menos a igualdad explíquenoslos por favor aunque yo creo que si no

dudo que la señora gorospe hoy por mucho que se saque conejos de la chistera vaya a poder aclarar algo pero si tanto les importa la igualdad entre hombres y mujeres tal y como dicen saben qué pueden hacer mejor

para hacer que este gobierno en vez de un miserable cero coma once por ciento del total del presupuesto destine por lo menos un cero coma cuatro del total del mismo a estas políticas y también les digo que no nos conformamos con eso no nos conformamos con un cero coma cuatro por ciento es solo un primer paso nuestra propuesta como sabrán es el aumento progresivo de estas partidas

el uno por ciento del total del presupuesto pero señora gorospe no es solo dar un salto cuantitativo en esta materia también es necesario dar un salto cualitativo

departamentos del gobierno vasco asuman un compromiso real con la igualdad y la erradicación de las violencias machistas y para eso también hacen falta partidas especificas en cada uno de los departamentos tal y como lo hemos hecho en elkarrekin podemos pero saben una vez más qué van a votar ustedes a esta propuesta que demanda el movimiento feminista

y eso sí luego nos volverán a contar lo importante que es para el pnv y el gobierno por eso han votado en contra de aumentar en veinticinco millónes de euros los recursos destinados a la igualdad y a lucha contra las violencias machistas otro ámbito en el que no ha llegado

millónarias del cupo y de los presupuestos más grandes de la historia es la educación aunque bueno corrijo a la educación pública porque a la privada vaya si les ha llegado

en el departamento de educación nos encontramos ante un presupuesto raquítico que no satisface las necesidades del sistema educativo vasco un presupuesto que fortalece los conciertos educativos y la privatización de la educación en detrimento de la escuela pública un presupuesto

cuando es la red pública la única opción que contribuye a la igualdad de oportunidades y a la construcción de una convivencia democrática solidaria y responsable y lo que ocurre en euskadi no ocurre ni en el estado español ni en el resto de la unión europea

el cien por ciento de la educación es de titularidad pública y ustedes con estos presupuestos refuerzan la existencia de dos sistemas educativos paralelos dos redes educativas que caminan a dos velocidad y además a dos velocidades distintas

tan de la derecha casualidades de la vida han aumentado la financiación de los conciertos educativos quién podría imaginarlo verdad saben además cuánto doce millónes de euros ahí es nada

forma que tiene este gobierno de apoyar la escuela pública aumentando

la financiación de las escuelas privadas y subvencionadas

ez bezala argi daukagulako diru publikoarekin eskola publikoa y así hemos creado diversas partidas presupuestarias entre las que me gustaría destacar hoy las destinadas a la construcción de nuevos centros educativos

y de primaria y de secundaria y a la puesta en marcha de obras de gran envergadura por valor de doce millónes de euros esos que ustedes destinaban a los conciertos y ahí están las diferencias entre lo que la señora mendia considera que es hacer políticas de izquierda y lo que consideramos nosotros y nosotras

en vez de aplaudir que se den doce millónes de euros a la escuela privada los proponemos a la escuela pública pero sinceramente tienen la posibilidad de votar a favor de nuestra enmienda está en su mano pero es que si esto fuera poco

apoyan al partido popular para que se regale a escuelas privadas elegidas a dedo

pero esto no acaba aquí es que aún es más grave este gobierno destina trece millónes de euros a seis colegios privados del opus dei colegios que por si fuera poco lejos de formar en la igualdad segregan por sexos niños por un lado niñas por otro zorionak eaj eta pse zorionak comparemos comparemos los veintiuno millónes

de verdad hablar de dos velocidades a veces se queda corto podríamos hablar tranquilamente de colegios privados que van en un fórmula uno

que va en un coche familiar al que este gobierno además le quita la gasolina para que no pueda competir pero no queda ahí la cosa

al fortalecimiento de la red pública educativa vasca a la creación de empleo o a una reorientación de nuestra política industrial no ustedes también han votado que no

a acabar con el incumplimiento sistemático de una de nuestras leyes salga adelante la de cooperación al desarrollo cuando algunas personas se empeñan en denominar a estos presupuestos los mayores de la historia pnv y pse votan en contra de aportar un cero coma siete por ciento a la solidaridad con los pueblos empobrecidos pero ustedes también han votado que no

siguen pese a que el pnv diga que ya no estamos en crisis

de ese mismo año cuando desvinculó la rgi del smi y esos presupuestos del país de la piruleta

cubrir con otra ley de este parlamento hoy el maná millónario del cupo no alcanza para que se cumpla la ley dieciocho barra dos mil ocho para la garantía de ingresos y la inclusión social pero saben para qué sí les han llegado estos millónes

para asesores y altos cargos ya no hay crisis pero ay amigo para políticas sociales educación y empleo

y es que además son ustedes tan cínicos que les parece una locura que en elkarrekin podemos planteemos una reducción del quince por ciento de los altos cargos de este gobierno saben qué sueldo mínimo tienen

sesenta mil euros para ellos no hay recortes

la que lo está pasando mal la que tiene sueldos precarios o pensiones de miseria para esos sí hay estrecheces

para esos no para esos no hay recortes pero para los que no llegan a seiscientos cincuenta para esos sí y les digo más

a petición del partido popular va a dar este gobierno ciento sesenta de las ciento ochenta presentadas por ellos son subvenciones nominativas subvenciones que se dan porque se cae simpático al pp y saben cuánto suman esas subvenciones a dedo dieciocho millónes de euros

que quiere una mayoría de vascos y vascas frente a las protestas en la sanidad y en la educación pública

en el momento en que la violencia machista repunta se rebaja en uno millón de euros la partida destinada a ello en el momento en que nuestra industria atraviesa una grave crisis y en el que el empleo es más precaria que nunca este gobierno simplemente

pasa palabra y hoy esos presupuestos no dan respuesta al cuarenta y tres por ciento de vascos y vascas que tiene

al cuarenta por ciento de vascos y vascas que les preocupa la calidad del empleo tampoco da respuesta al veintidós por ciento

ni al veintiuno por ciento preocupado por la situación económica hoy estos presupuestos no ayudan al setenta y tres por ciento de vascos y vascas que creen que euskadi

ni va a hacer cambiar de opinión al setenta y nueve por ciento de vascos y vascas que cree que las cosas no van mejor

a esa minoría que sí ha salido de la crisis y le va bien estos presupuestos les parece una fiesta la fiesta organizada por el partido popular

pero la mayoría de la sociedad vasca ni está ni se la espera

hoy a pocas horas de que el independentismo y la república de cataluña obtuvieran otra clara victoria

es un buen día para hablar de presupuestos unos presupuestos del gobierno vasco avalados por los partidos del ciento cincuenta y cinco aquellos que intentan liquidar

ateratzen ditu pnvk y decir lo contrario es faltar a la verdad señorías porque los partidos del ciento cincuenta y cinco contra el autogobierno en cataluña son los mismos partidos que niegan el desarrollo del autogobierno aquí porque los partidos del ciento cincuenta y cinco que liquidan

el independentismo en cataluña los partidos del ciento cincuenta y cinco que dicen que cataluña es un país enfermo y que hay que desinfectar esos partidos

pacta aquí pero dice que no habla de presupuestos de momento

son los que han cortado el autogobierno vasco son los que han desdibujado y limitado por la puerta de atrás muchas de las competencias transferidas son

incumpliendo sus propias leyes porque ellos mismos

que ya vivimos lo suficientemente bien como para liarnos con esas cosas estos presupuestos por lo tanto son los presupuestos del conformismo del conservadurismo del seguidismo al estado porque los apoyan los que imponen reformas laborales en contra de los y las trabajadoras

los que incumplen sistemáticamente sus acuerdos de estabilidad en europa pero son capaces de imponer

sus límites a los demás los que tienen a miles de personas dependientes desatendidas porque la política social es su prioridad una vez más no van a responder a las necesidades de la sociedad vasca ni en materia de protección ni en materia de empleo ni en materia

estos presupuestos son más de lo mismo unos presupuestos para continuar con acciones

y lo más triste es que van a dejar otra vez a gente desatendida una vez más no van a parar la sangría de cierre de empresas que sufrimos y de nuevo

de un estado que se ha demostrado fallido en vez de hacerlo hacia modelos de países avanzados eta hau guztia hau zuen autua da

han metido en el mismo saco la negociación presupuestaria y la política fiscal algo que parecía impensable que parecía casi un sacrilegio por su parte esta vez para pactar con el pp ha sido coser y cantar otro claro ejemplo de incoherencia de este gobierno miren en el presupuesto de dos mil diecisiete le dijimos al señor azpiazu con claridad que aquello que aquel presupuesto nacía lastrado

de una contrarreforma fiscal diseñada por las clases más pudientes y los técnicos de confebask

decidieron esperar sin articular medida ninguna aun cuando se lamentaban de la insuficiencia

les dijimos que era otro año perdido y que su acuerdo con el pp era presagio de más años perdidos porque ya entonces el partido popular dejó bien claro

punto de su acuerdo era la política fiscal y por lo tanto nada bueno esperábamos de aquello y no nos equivocábamos y hoy volvemos a tener un presupuesto que aunque el gobierno lo ha clasificado como el mayor presupuesto con el que ha contado nunca el gobierno vasco

no es como para lanzar cohetes o como diría el señor consejero azpiazu no da para muchas alegrías

le quedan unos cuantos años tristes señor consejero porque evidentemente unos presupuestos con casi doscientos millónes menos disponibles que en el dos mil nueve

que se cubrían entonces porque unos presupuestos con escasos doscientos noventa millónes más que el ejercicio diecisiete son unos presupuestos

y así por ejemplo nos encontramos con casi ciento diez millónes menos en educación que en el dos mil nueve y luego algunos todavía tienen la cara de escandalizarse y de criticar las movilizaciones del mundo educativo por la defensa de la educación pública

de la suficiencia presupuestaria pero se contradicen ustedes mismos cuando nos cuentan no hay dinero para más anuncian

del crecimiento pero se olvidan de que eso no llega a la mayoría de los hogares de este país

esas políticas que han alimentado que cada vez esta sociedad sea más desigual acaso existe el modelo de país que nos quieren hacer llegar

y con índices del pib similares al dos mil ocho todavía hay más hay setenta mil personas menos ocupadas que antes de la crisis

son temporales el treinta y dos por ciento de las personas que trabajan lo hacen con un trabajo eventual y un veinticinco por ciento de las personas trabajadoras tienen trabajo

así que esta precarización del trabajo hace que haya trabajadores pobres trabajadores pobres

porque son uno de cada cinco perceptores

es la estadística de los ingresos netos medios percibidos por los hogares que según la encuesta del ine espero que se la creerán ascendía en el dos mil dieciséis a treinta y cuatro mil cincuenta y cuatro euros más de dos mil euros menos que en el ejercicio dos mil ocho

y esta situación señorías esta situación no es fruto del azar no es consecuencia solo de la crisis económica sino de las políticas públicas que ustedes deciden

en ellas porque son ustedes quienes se escudan en la crisis para amparar la precariedad los salarios más bajos y los recortes en políticas sociales en definitiva la desigualdad son ustedes los del trimonio

a llegar con una pensión mínima a su jubilación después de haber trabajado media vida

se han encargado de expulsarlos del mercado laboral son ustedes

los contratos parciales los despidos casi gratis para que los grandes empresarios cada vez ganen más en definitiva ustedes los de la vuelta a la esclavitud encubierta los del matrimonio de conveniencia con amantes en otros lugares que les siguen llenando la cartera y son ustedes los del no hay para más mientras les bajan los impuestos a los que más tienen

a aquellos que pusieron patas arriba el sistema bancario

eta horrela ez daukagu haratago joateko aukerarik euskal herri honetan porque este presupuesto una vez más saldrá adelante gracias al partido popular

entre las consejerías de unos y otros no se han tocado porque básicamente lo que el pp ha tocado es el crédito global es decir dinero

un destino definido porque vuelven a plegar los intereses de la ciudadanía vasca a la negociación arbitraria de cada navidad a escribir la carta a los reyes magos situados esta vez ya sin complejos en el palacio de oriente mientras el olentzero sigue sacando carbón con el sudor y una vez más todos se cobran su parte porque reparten dinero

asociaciones afines y aquellos ayuntamientos donde gobiernan o aspiran a ello ya existían muchas de estas partidas en el presupuesto presentado por el gobierno fruto de esos equilibrios que he comentado entre el pnv y el pse

las del partido popular hoy hoy ustedes visten las enmiendas que han aprobado como buenas para la sociedad en general reforzadoras de las políticas sociales de la creación de empleo y del desarrollo del país pero lo que no dicen

es que entre esas enmiendas más del noventa por ciento son nominativas es decir que no son para reforzar las políticas públicas directas del gobierno para repartir dinero entre asociaciones casas regionales o centros educativos privados por muy loable que sea el trabajo de muchas de ellas

a sumar lo que ya se embolsan las fundaciones del pnv del pse también

y no dicen que destinan más de seis millónes a ayuntamientos o juntas administrativas donde gobierna el partido popular resultando incluso que algunos de estos también recibirá un buen de los presupuestos forales alaveses también por medio de enmiendas del partido popular

veinte por ciento de los treinta millónes del partido popular de las enmiendas del partido popular son para municipios donde gobierno el partido y sin tener en cuenta en este porcentaje el millón de euros que ustedes asignan a vitoria menos mal que ustedes gobiernan en muy pocos sitios menos mal y podríamos seguir podríamos seguir largo y tendido enmiendas

en ninguno de los múltiples planes que ha presentado este gobierno enmiendas que no se enmarcan en las estrategias de los departamentos de este gobierno

se enmarcan dentro de una estrategia por ejemplo por el empleo que podría haber presentado el partido popular pero no son enmiendas que solo siguen la lógica de repartir dinero siguiendo los dictados del partido con el que han pactado

les da igual que sea para cuestiones que no son competencia de este gobierno o que esto parezca más el sorteo de la lotería de navidad que unos presupuestos eso a ustedes les da igual hoy sacarán los presupuestos adelante presupuestos apoyados por los del ciento cincuenta y cinco por aquellos que no solo liquidan gobiernos en cataluña

no dudan en hacer avisos a navegantes como hizo recientemente el ministro zoido y su el ciento cincuenta y cinco

cuando se le preguntaba solo por competencias sin transferir estos señores del gobierno estos son sus apoyos con estos van a construir ustedes

que lo dude porque existen al menos ciento cincuenta y cinco razones para construir un bloque alternativo al del bloqueo madrileño al de los palos el uno de octubre en cataluña y sobre todo un modelo diferente

con la que se tratan de atajar los problemas de la clase media y de los más desfavorecidos gaur berriz ere aurrekontuak aterako dituzue pse

zuek eroso a la espera de que al pp le vuelva a tocar la lotería

que pasando por barcelona por cataluña ahoga también a nuestro pueblo un hilo que se cose con la represión desde la calle génova y que pasando por las cárceles llega con mucha holgura demasiada holgura a estos presupuestos

necesitamos que abandonen el ciento cincuenta y cinco y que vengan de una vez por todas a construir un país mejor un país para todas

eh bildu dago zurituta dago pekatua eso es tener mucha jeta lo que no se puede lo que no se puede es juzgar una misma acción como vicio cuando la hace el adversario político y como virtud cuando lo hace uno mismo porque está eh bildu entonces ya hemos blanqueado todos los pecados zintzoa izan behar da

el cinturón soltatuko dugu nos inventamos un objetivo y ya está hombre

faltsukeri hutsetan ibiltzea da al señor damborenea que creo

le respondo hernández jauna egun on quienes han dicho que no

han dicho que no a reforzar políticas de igualdad han dicho que no a reforzar políticas de acción positiva en comarcas desfavorecidas han dicho que no a favorecer la cooperación ustedes ustedes han dicho que no

la posibilidad de haber llegado a un acuerdo con el gobierno la han tenido ustedes también indudablemente el gobierno ha presentado un presupuesto

para nosotros eso que ustedes dicen de manera despectiva continuista para nosotros es una virtud porque es dar continuidad a un programa de gobierno que empezó a materializarse cuando el gobierno se constituyó

han tenido posibilidades de llegar a un acuerdo con esa capacidad que podían tener de poder apoyar el presupuesto y no lo han hecho

y si ustedes lo que están diciendo es claro ustedes llegan a un acuerdo con el partido que menos representación tiene

nosotros necesitamos un voto o una abstención una abstención ni siquiera tenían que haber apoyado los presupuestos zuen abstentzioa izan bagenu

huya de estereotipos y fíjese en los hechos

si hubiera realmente un sistema de educación a dos ritmos se notaría la diferencia le propongo un ejercicio

nabarmena balitz igarriko litzateke bueno tapia que no le pille por sorpresa qué quiere que le diga

a pillar por sorpresa pero tal vez a ustedes sí les pueden pillar por sorpresa muchas cosas porque la verdad es que si es alguna acción en contra del gobierno

pero en otras infinidades de actividades de actuaciones de propuestas de iniciativas de jornadas que se van organizando a lo largo de la actividad y de la vida de este país

muchos y muchos de ellos es muy difícil verles sino es que es una acción expresamente preparada para azotar al gobierno vasco

impulso a los proyectos tractores y estratégicos apuesta por la

empresarial creación de un ecosistema que favorezca la competitividad para la formación y capacitación de las personas para la industria cuatro punto cero guzti horretarako

y bueno es una satisfacción si es una satisfacción será porque malo no es

y si vamos a los gastos por programas de departamentos que tiene tres grandes apartados vemos que el primer sector edo lehenengo sektorea tiene ciento treinta y siete millónes

cuando la proporción de empleo y del pib que genera cada uno no es evidente

y además debe ser así la lectura que hay que hacer de esto es que se ha cronificado y no parece que podamos salir de esta espiral seguimos en la espiral del apoyo y de las subvenciones bi gauza

ekilibratu nahi dituela es un presupuesto que pretende llegar y alcanzar un equilibrio apoyar positivamente con acciones positivas aquellos sectores personas y territorios que mayores dificultades tienen en relación con otros por razones socioeconómicas por razones de género por razones

por razones diversas se necesita apoyar prioritariamente y una segunda reflexión y esa va dirigida a ustedes

no se han atrevido a apoyar el presupuesto a pesar de que podían haber reforzado esas políticas que para ustedes tanta importancia tienen porque ninguno de ustedes ni eh bildu ni elkarrekin podemos han presentado

que supongan un cambio de orientación de los presupuestos para nada

unas enmiendas que lo que hacen es incrementar partidas en salud en educación en políticas sociales en zonas desfavorecidas en igualdad sí señora arana pero es que lo podían haber hecho eta zuok berdin beste politika batzuetan

ustedes tienen el riesgo de cronificarse en la oposición ustedes pueden cronificarse y eso es un riesgo muy importante en algún momento dado tendrán que tomar la decisión si quieren dar un paso más

o entrar en la espiral de la oposición y cronificarse en ese rol hori zuen erabakia izango da señor damborenea antes iba a empezar con usted más que nada tres ideas

a las decisiones desde luego está claro que no son sus presupuestos usted lo ha dicho muchas veces claro y tampoco sus enmiendas todas son de nuestro gusto pero nosotros tenemos un acuerdo con ustedes y vamos a ser leales como ustedes eran leales a nuestro acuerdo por lo tanto hay ámbitos de discrepancia que son absolutamente razonables y son pues eso los pelos en la gatera que hay siempre discutimos los ponemos aquí algún día nos vamos a quedar calvos de tanto

hacerle dos observaciones en relación a otros ámbitos que ha mencionado uno

que es un gobierno con falta de rumbo y se refería al ámbito de paz y convivencia decía usted que no lo entienden tal vez si su rol fuera un rol activo

hicieran por participar por contribuir por escuchar por hablar por aportar

mucho mejor pero esa es nuestra tarea es la del parlamento vasco no eche la responsabilidad al gobierno vasco de lo que es nuestra responsabilidad y un segundo ámbito también

y es hacer los informes que desde la ponencia del gobierno vasco se le han requerido nos los ha enviado y somos nosotros los que tenemos que avanzar a ver si ahora va a resultar que el gobierno tiene que

todas las penas todos los suspensos que nosotros en su caso podríamos tener porque eso tiene que ser muy cómodo siempre tiene que haber un culpable igual es por nuestra tradición católica que necesitamos un culpable

siempre y además por nuestra naturaleza egoísta como humano ese culpable siempre es alguien ajeno a nosotros eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

no lo he visto ni yo ni mi grupo cuando hablamos de falta de rumbo yo le voy a hacer una pregunta luego si quiere la contesta o no usted cree que es coherente decir

que podían pactar con nosotros con bildu con podemos con todo el mundo porque da igual o sea de verdad presentamos los mismos proyectos

es indiferente yo creo que no yo creo que no

y eso es una demostración a mi entender de falta de rumbo si por lo visto bastaba una abstención de bildu o de podemos o de lo que sea

pues yo creo que ahí tenemos un problema o podemos tener un problema

dos cosas muy simples la reforma fiscal primero esto de confundir las rentas de capital con el impuesto de sociedades mal y segundo que beneficia las grandes empresas oiga créanles a ellos no a nosotros

qué han dicho que beneficia a las pymes el acuerdo al que hemos llegado pero lo dicen ellos los dicen los empresarios no nos crea a nosotros créanles a ellos por qué le van a engañar no tiene ningún sentido pero le voy a recordar hace siete meses

fue que si venía una reforma fiscal porque se hablaba de la reforma fiscal no porque estuvieran en marcha la reforma fiscal nosotros queríamos participar y acordar esa reforma fiscal y el señor consejero lo sabe

y esta vez ya lo dejo es imposible defenderle al señor consejero

no soy yo el que va a tener que salir a defenderle pero señor bollain la red concertada

mire usted del opus o no del opus me da absolutamente igual para su información

están en la pública y en la concertada para su información los vascos de nuestros impuestos nos gastamos el doble en financiar a la pública

solo para su información pero es que encima he llegado a entender que por lo visto la concertada va como un tiro y enseñan fenomenal y la pública

a lo mejor siguiendo su argumento tendríamos que ir todos a la concertada

y segundo le voy a decir una cosa porque usted no hace en educación un discurso y en sanidad nos hace el contrario

nos presenta enmiendas para que clínicas privadas las asuma

lo que vale en sanidad no vale en educación o qué sistema o qué modelo están planteando o depende lo que toque en cada caso digo una cosa y digo la contraria sí sí subvenciones nominativas podríamos estar todos de acuerdo aquí que no haya subvenciones nominativas en los presupuestos y que ningún grupo presente enmiendas

que ustedes también las presentan estos señores también las presentan por cierto en algunas coincidimos con ustedes y con ustedes y ustedes nos aprobaron la mayoría de ellas hace seis meses no me venga haciendo esta trampa de las subvenciones nominativas

por ejemplo en euskaltzaindia que antes no lo he citado a ver si dejamos de hacernos trampas en el solitario

pero entonces suprimimos todas las nominativas que vienen ya en el presupuesto señora

felicitando a los catalanes yo si quiere se le voy a felicitar a los vascos creo que los vascos hemos tenido un año bastante mejor que el de los catalanes que nos ha ido bastante mejor

pues también nos venga mejor que a los catalanes fíjese que creo que va a ser fácil que nos vaya mejor que a los catalanes ahora

en fin como algunos estábamos allí aquel presupuesto de dos mil nueve en el que se cayó la recaudación y los impuestos un veinte por ciento que hubo que autorizar deuda al gobierno vasco de dos mil millónes para pagar a los funcionarios

cifras de aquel presupuesto en fin con el voto en contra suyo por cierto y de su grupo comparar aquel presupuesto con estos pues es como en fin claro hoy en este presupuesto la mayor partida

en aquel presupuesto el pago de la deuda yo no sé si llegaba a doscientos millónes por ahí andaba no recuerdo bien pero por ahí andaba

viene esto de aquello y del diez y del once y del doce y del trece entonces

y yo estoy de acuerdo con usted que una de las cosas más preocupantes son los ingresos netos de las familias nos dice usted son menores que en el año dos mil ocho y le tengo que dar la razón y eso responde a dos cosas a la crisis económica

y a la subida del irpf que se hizo en el trece claro claro y a la subida del irpf que se hizo en el trece por lo tanto

claro se lo dije ayer ustedes quieren que las familias tengan más renta disponible vamos a bajarles el impuesto del irpf y así tendrán más renta disponible porque la renta disponible viene porque se gana más

fácil se la dije ayer a su grupo se la dije a podemos y desde luego a nosotros en esa vía nos van a encontrar es posible hasta que lleguemos a algún acuerdo

tradicionales o clásicos y la comparativa de los reyes magos y el olentzero

la lotería de navidad no me ha tocado nunca por lo tanto no me los equipare y alguna vez han traído carbón no sé si lo sacaba el olentzero o no lo sacaba con el sudor de su frente el carbón que traían los reyes magos pero en cualquier caso

está de suerte y ha encontrado novia este año por lo tanto

una feliz navidad y que el año que viene sea mejor que este para todos muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak

señor antón damborenea que todavía día nos puede tocar

posibilidad es lo que pasa cuando en una tribuna se habla de impuestos a la ligera el señor damborenea nos propone

elkarrekin podemos y eh bildu no tienen más que brocha gorda en el discurso de la fiscalidad

una y otra vez la cuestión de las modificaciones en materia fiscal que se van a poner en marcha para el ejercicio dos mil dieciocho pues parece ser que no tenemos predicamento entre ustedes entonces a mí se me había ocurrido un poco verdad ayer como estuve un poco de cuchibirillo pues voy a hacerlo un poco yo a lo vasco es decir le apuesto cien euros ahora a usted

a que la recaudación por el impuesto de sociedades con la reforma que se va a realizar va a tener más recaudación para seguir sosteniendo los servicios públicos de educación de sanidad y de protección social del gobierno vasco si usted me acepta la apuesta cuando baje que viene detrás mío y tendremos la paciencia suficiente para esperar a la recaudación y ver cómo se comporta

porque usted solo se ha querido fijar en una cosa que es la que le interesa para ese discurso encendido que nos viene hoy a hacer aquí en el que le ha gustado o les gusta más

más que de cuestiones económicas o de cuestión de programas de actuación

no hablen solo del tipo nominal no hablen solo del tipo nominal salvo que me reconozca aquí también en tribuna que es que no tienen ni idea de cómo funciona el impuesto de sociedades y de lo único que pueden ustedes hablar

que tengan un abanico mayor de prensa en el que se puedan fijar porque

y ya lo va usted interiorizando no sé si sabe lo que significa la palabra acuerdo

maravillosa propuesta vamos totalmente envuelta en celofán y con luz de brillo pero esa es su propuesta cuánto votos tiene usted cuántos

necesita tener capacidad de acuerdo y no tienen capacidad de acuerdo y por tanto no tienen capacidad de influencia eso es lo que le pasa ese es el pasapalabra en el que están ustedes en este momento desde que llegaron al parlamento vasco pasan palabra cuando hace falta mojarse y su hoja de ruta como lo dijo muy bien su recién elegido secretario general

cosas que se marcan con objetivos muy concretos y con convicciones muy firmes que yo en ustedes de momento

no me gusta tener que hablar de que puede haber ignorancia populismo o cinismo

que se hacen pero decir que no hay ni un euro de apoyo en la naval de sestao

que no es perdonable en una tribuna pública porque usted sabe perfectamente

de que el gobierno vasco nos ha explicado perfectamente y no solamente el gobierno vasco sino también los sindicatos que comparecieron del comité de empresa

de los contratos de los barcos para la construcción porque avalan esos contratos y sin ser esa financiación que aporta el gobierno vasco ellos no podrían cerrar los contratos entérese un poquito antes de hablar y por eso por mucho que aquí diga

vamos a ver si en algún momento además de hacer participación tenemos medidas saben perfectamente porque también se les ha dicho se lo ha dicho la señora gorospe que existen ya partidas y que se está trabajando desde diferentes departamentos en todas las comarcas

con brocha gorda y el presupuesto desde luego no es un brindis al sol no es un brindis al sol y no le voy a cruza otra apuesta pero

el año que viene vendremos aquí y tendremos menos desempleo y eso será un dato objetivo y eso no es un brindis al sol eso es un

discurso maniqueo de la inspección de trabajo cuando les hemos explicado y me dicen que no tenemos

de trabajo y justicia un objetivo claro en la lucha contra los accidentes laborales es también desconocer lo que se le ha dicho y lo que se le ha explicado en comisión de economía y es que en este momento hay treinta y ocho inspectores la cifra más alta de la historia de la inspección vasca que contamos con trece subinspectores y que en este momento el objetivo que se marca el gobierno vasco en esos presupuestos que hemos presentado es la creación de seis plazas de subinspector

de prevención de riesgos laborales para evitar o para poder en su momento poder

desde el gobierno vasco en evitar que haya accidentes laborales

leer a medias cuestiones que dice usted que dicen verdad algunos

un discurso o justificar el inmovilismo o la incapacidad que tenemos

de otros grupos y hay una cuestión que a mí también la verdad es que me molesta me molesta saber y me gustaría que me contestara por qué

en el gobierno que gestiona con competencias ejecutivas no puede cobrar lo mismo que usted y yo cobramos en este parlamento por qué su sueldo sí es correcto y el sueldo de un director del gobierno vasco es excesivo si cobramos lo mismo yo creo que

por tanto no hagan tampoco demagogia en esta cuestión porque con este tema

vale para que no todo el mundo pueda tener la capacidad de estar y defender a los ciudadanos en una cámara con respecto

con respecto a la señora leire pinedo que ha intervenido en nombre de eh bildu pues la verdad tampoco me sorprende o sea nos ha empezado en catalán vamos

me hubiera dejado totalmente impactada y eso que hoy me cuesta vamos reaccionar yo

de dónde hoy este año no ha tocado explicar ni del tav ni de la ertzaintza claro yo ya entiendo que no lo hagan porque en

vamos nos han quitado y tiene usted al lado a la señora jone goirizelaia nos han quitado o han pretendido decir que quitáramos las partidas de los sistemas de protección telemática de las víctimas de violencia de género

gobierno destina a la protección de personas sabe usted que la protección de personas o la partida de protección de personas tiene que ver con las escoltas

está muy bien salir a esta tribuna pedirnos a todos que hagamos muchos esfuerzos al departamento de justica al departamento de seguridad y luego

que a nosotros nos interesa mucho más una oficina internacional para explicar que queremos la independencia y para eso dos millónes para proteger a víctimas

no lo compartimos y además me alegro de no compartirlo ya le he dicho en mi primer turno que yo iba a estar muy orgullosa de votar en contra de algunas de las enmiendas que ustedes habían presentado mire

nunca jamás excepto en el país de nunca jamás en el que ustedes están viviendo existirá un presupuesto que no tenga un límite ustedes han gobernado saben lo que eso significa el dinero llega hasta aquí

que el año pasado sí se han dotado más

se han dotado más recursos para sanidad se han dotado más recursos para protección social

me tendrán que reconocer que este año en la comunidad autónoma hay más dinero destinado a esas cuestiones

más dinero porque este parlamento va a aprobar un presupuesto con la capacidad de influencia que tiene el partido socialista por mucho que alguien le moleste yo ya sé me ha dicho usted que había asuntos que no eran imprescindibles que habían hecho enmiendas

de los centros de menores que no hacía falta tener seguridad tampoco en los juzgados por cierto

para hacer materia de formación esa formación que luego exigimos porque nos dicen que no hay que revictimizar a víctimas que luego exigimos que

el dinero o los recursos necesarios para que esa formación la puedan recibir bueno esa es la coherencia usted ha dicho que esos son asuntos que no son imprescindibles no son necesarios para esta sociedad pero que sí hay otros

y ha sido en concreto se lo he dicho yo tres coma siete millónes para las obsesiones independentistas del país de nunca jamás en el que a ustedes les gusta vivir
pues como verán así va a ser difícil que lleguemos a un acuerdo eskerrik asko castelo andrea elkarrekin podemos bollain jauna zurea da hitza

eskerrik asko señora gorospe continuista no regresivo

hoc para la patronal y nosotros dónde estamos estamos en la calle mientras otros están en inauguraciones haciéndose fotos

a mi compañero uria nuestro problema es cuánto se gasta y dónde se gasta porque ustedes

nosotros apostamos por lo contrario apostamos por reducirlas decía la señora castelo que no está aquí sobre los inspectores de trabajo es verdad

pero es que sigue seguimos por debajo del ratio

recomendado por la oit tenemos el doble deberíamos incrementar el doble la cantidad de inspectores de trabajo para llagar al ratio de la oit y la verdad es que uno escucha al pse

y sinceramente los que tienen un problema de coherencia son ustedes

son ustedes los que firman pactos de la vergüenza y no es que seamos nosotros lo reconocen ustedes mismos la señora mendia lo llama pactar sin prejuicios confundiendo los prejuicios con los escrúpulos y con los principios he dicho que es su problema pues me he equivocado es el problema de la gente que votó su programa es el problema de una mayoría social a la que perjudican sus pactos

en el que no venían precisamente rebajas de impuestos a la patronal ni financiar a colegios del opus ni transferir recursos de la educación pública a la privada

ni negarse a dotar con mayores recursos la lucha contra la violencia machista pero es eso lo que van a hacer

hablaba la señora gorospe de la industria vasca y tengo algo que decirle

también planteamos un fondo para empresas en dificultades para esas empresas que el gobierno no tiene respuesta

y dicen que es ilegal ayudarlas pero es falso le hemos pedido a la señora tapia en reiteradas ocasiones los informes jurídicos al respecto y no nos ha entregado ninguno porque no existen señora tapia no existen y hablan de coherencia ustedes en el pse hay que tener valor entre lo que decía el señor patxi lópez hace cuatro años sobre fiscalidad en esta misma tribuna y lo que ustedes han firmado hoy porque hay un abismo un abismo además pero mire se lo hemos dicho ya estos días tienen nuestra mano tendida para llegar a acuerdos tienen la mano tendida pero no para llegar a cualquier acuerdo o a cualquier cosa la tienen tendida para hacer políticas progresistas junto al resto de las fuerzas progresistas y la decisión es suya no nuestra y como es suya

la responsabilidad de sus pactos son ustedes los que llevan meses negociando este acuerdo tantos meses como los que se han pasado desde que en mayo

el señor rementeria dijese que se iba a bajar el impuesto de sociedades dice la señora gorospe

que tenemos que aprender a pactar como hacen ustedes como hace el pnv que tenemos que priorizar cuatro cositas a cambio de apoyarlas

echar la culpa a podemos para tapar sus vergonzantes pactos con un partido popular corrupto centralista antisocial y neoliberal pero es cosa suya de verdad

no es su tamaño es que la inversión en relación

está en mínimos históricos mientras están en máximos el gasto en asesores y en altos cargos

lo que no se invierte en políticas sociales y ese es el problema de estos presupuestos que son malos que son verdaderamente malos malos para ese setenta y tres por ciento de vascos y vascas que creen

malos para ese setenta y nueve por ciento de vascos y vascas que cree que las cosas no van a mejor y son fantásticos para la minoría que le va bien son buenos para los seis colegios del opus dan brincos de alegría son buenos para la sanidad privada

menos impuestos aún de los que pagan hoy en día señora gorospe señores del pnv

como dijimos la semana pasada que estos sí son competencia exclusiva de este gobierno en los que hay hoy en día se están dando clase en barracones y sí sé que es duro decirlo pero para nosotros

que hace este gobierno por la escuela pública deja a niños y niñas estudiando en barracones por poner dos ejemplos ahora mismo se está dando clase en barracones y en aldaialde ese es al euskadi del siglo veintiuno que quieren ustedes la nuestra no y sabe que el instituto de san adrián el aparcamiento se ha convertido en patio

sabe que en el colegio de miribilla hay humedades en las aulas

los niños que estudian en jakintza duermen la siesta entre humedades y recogen diez minutos a pie para ir al comedor o para ir al gimnasio cómo es posible que con la millónada de la que presumen

nuestra educación pública siga así cómo es posible que teniendo la mejor financiación del estado no haya una prioridad por la educación pública cómo es posible que estén ante una huelga dura de trabajadores y trabajadoras de la educación pública y ustedes den doce millónes de euros más a los colegios privados

es un problema de prioridades señora gorospe es un problema de para quién gobiernan ustedes y lo hacen para los colegios privados lo hacen para la red concertada y ese es el problema y claro que necesitamos más recursos pero hay que empezar por gestionar bien los que se tienen hoy en día si estos son los mayores presupuestos de la historia de euskadi cómo es posible que no haya dinero para revertir los recortes de la rgi porque no se cumple la ley dieciocho barra dos mil ocho hay recortes cómo es que no haya imposible que no haya dinero para mejorar la lucha contra la violencia machista y que se reduzcan en uno millón la partida en qué se está gastando el dinero señora gorospe en a precio de oro en altos cargos y asesores en darlo a dedo

en transferirlo a la educación y a la sanidad privada en obras megalómanas y saben lo peor de todo ahora señora castelo y señora mendia casualidades del destino no están en ninguna de las dos ah perdona saben qué es lo peor pues señora mendia

que hoy ustedes están votando en contra de su conciencia hoy ustedes votan no a nuestras enmiendas

no porque crean que son malas hoy ustedes votan en contra porque ustedes han pactado con el partido popular que iban a tumbar las enmiendas del resto de la oposición sean las que sean aunque estas sean

aunque sea para mejorar la vida de muchos vascos y vascas el problema es que ustedes son rehenes del partido popular de sus pactos con el partido popular hoy ustedes votan no no porque no sean incorrectas nuestras enmiendas sino porque es el pago que les ha exigido el partido popular

lo va a negar la señora castelo no creo y eso se llama incoherencia y ahora vuelven o ahora vuelvan ustedes a tener los arrestos de decirnos que el problema lo tenemos nosotros en elkarrekin podemos ha dicho la señora castelo

y ha resaltado que el partido popular ha sabido utilizar su capacidad de influir señores y señoras del partido socialista de euskadi dónde está su alternativa dónde está su capacidad de influir

con tres departamentos que cuentan del total del presupuesto solo tienen un tres coma nueve por ciento solo un tres coma nueve por ciento en tres departamentos del total del presupuesto

ni tienen capacidad de influir en este gobierno porque han renunciado a ser alternativa ustedes han renunciado a ser alternativa para influir en conseguir una alternativa real

ustedes escriben su programa electoral con bolígrafo rojo

acaban firmando acuerdos con bolígrafo azul en nombre

el azul de las reformas laborales al azul del ciento treinta y cinco el azul del ciento cincuenta y cinco el azul del no es no el azul de las rebajas fiscales el azul de los recortes en la rgi de los recortes en la lucha contra la violencia machista en definitiva

con el que trazan y con el que marcan el trazo

y se equivocan ustedes se equivocan porque el problema está en su bancada el problema está en que han perdido el rumbo pero allá ustedes

bai la verdad es que escuchar al señor

decir cosas como que el gobierno tiene falta de rumbo y la incoherencia de su gobierno la verdad es que a una

damborenea algo que usted ha dicho me puede alegrar porque firman ustedes con aquellos que le dicen que ustedes no tienen rumbo porque firman ustedes con aquellos que les dicen

y es más todavía ustedes vienen aquí a decirles que tampoco a ustedes les gustan todas sus enmiendas pero todas a la buchaca todas a la buchaca

o el pp o eh bildu ustedes salen a la plaza del pueblo y llaman a la subasta

apertura de plicas subasta y aquel que tire la oferta más baja se lleva el gato al agua y eso es lo que hacen ustedes eso es lo que hacen ustedes ni principios ni dirección ni coherencia ni nada por el estilo simplemente subasta el partido nacionalista vasco con los presupuestos

o unos apaños pues lo metemos qué más da total todo es bueno para el convento como diría aquel miren con quién pacta el pnv el futuro de este país

mañana pactarán los presupuestos de madrid con un noventa y nueve por ciento de probabilidades pactaron la regla del gasto al día a los seis meses dicen que aquella regla de gasto no era del todo buena coherencia hombre por favor

y ahora nos vienen a decir que es que quizá no estaba del todo bien

avalado todas las políticas del partido popular en madrid que a ustedes les han interesado para intereses propios de su partido y evidentemente cuando habla el señor damborenea de la renta disponible la bajada de impuesto pues evidentemente

tan miserables que la renta disponible de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país no llegue ni para llevar una vida digna pero eso es lo que ustedes quieren como bien les ha recordado un sector público más delgadito y ustedes pactan con ellos constantemente pactan con ellos el partido socialista pues bueno parece que la portavoz no tiene muchas ganas

se quedará así porque evidentemente no le interesa no le interesa porque lo único que le ha interesado hoy aquí

y poner que las enmiendas del partido popular eran buenas es decir el partido socialista una vez más diciendo que lo que pone el partido popular encima de la mesa es de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior esto es lo que ha venido a hacer hoy aquí el partido socialista el partido socialista que en quince días

y se saltó su propuesta fiscal el partido socialista

como bien ha dicho el señor bollain menos de un cuatro por ciento del presupuesto de este gobierno vasco y tiene la poca vergüenza de decir que los demás no cambiamos el rumbo del presupuesto con estas enmiendas venga ya hombre con menos de cuatro por ciento venga ya sí sí sí se pueden hacer porque ustedes en ese cuatro por ciento tienen mucho de presupuesto que saben que es capítulo

con lecciones y el resto de preguntas que me ha lanzado la señora castelo pues evidentemente

porque evidentemente ella no quiere escucharnos yo le he escuchado atentamente cosa que ella no ha hecho

recortes en las políticas sociales impuestos por el partido socialista ese que al parecer da la patina de izquierdas a las políticas de este gobierno el partido nacionalista vasco niega el incremento el año pasado de la renta de garantía de ingresos cumpliendo la ley es decir el partido nacionalista vasco es quien incumple la ley sobre renta de garantía de ingresos es el partido nacionalista vasco a sabiendas pero lo hace porque evidentemente esa es su manera de ver la vida

tan maravillosas en algunas diputaciones poniendo en la picota a gente que recibe ayudas sociales ese es el partido nacionalista vasco

el presupuesto ha tocado hueso o sea vamos a ver tiene músculo o ha tocado hueso la realidad es que

sigue teniendo menos dinero disponible que en el dos mil nueve señor damborenea dinero disponible que yo ya me había encargado de restar la deuda que sabe usted muy bien

ustedes disponen de menos dinero disponible que en el dos mil nueve y todavía vienen aquí a decirle a la gente que se están cubriendo sus necesidades sociales sanidad

y la sociedad tiene muchísimas más necesidades hoy que en el dos mil nueve pero ustedes siguen como dice un compañero mío tú tira pa lante tira pa lante que ya llegará tira pa alante y así siguen ustedes tirá pa alante esa es su estrategia

ustedes encuentran estos compañeros de viaje esos compañeros de viaje con los que usted sabe que jamás va a construir

porque no lo quieren porque no es su proyecto porque su proyecto es otro su proyecto es españa su proyecto única y exclusivamente es españa y ustedes

ustedes es con ellos con quienes pactan el futuro de este país con aquellos que solo creen en el proyecto de españa con aquellos del ciento cincuenta y cinco sí del ciento cincuenta y cinco no estoy obsesionada es que ustedes ayer el ciento cincuenta y cinco pum entiende

sí sí ustedes aquellos que dicen que gracias a ustedes pues bueno la estabilidad de este país es mucho mejor y vivimos mejor que los catalanes usted sí vive mejor que sus compañeros catalanes eso sí usted sí

no vaya usted a comparar su sonrisa con la del señor albiol hombre por dios vaya usted a comparar pero hasta ahí

porque ustedes lo digan porque su estabilidad es la estabilidad de no moverse su estabilidad es la estabilidad de no avanzar

es la de negar el derecho de este pueblo de aspirar a ser algo más ese es su modelo de estabilidad eso es lo que ustedes quieren y estos señores y señoras se lo van en bandeja porque estos señores y señoras se encuentran cómodos jugando

en ese mercado ese es el problema de este país y eso es lo que tenemos y ya acabando sinceramente hoy el día después de la derrota del ciento cincuenta y cinco claro que probablemente como dijo el señor zoido pues habrá ciento cincuenta y cinco para rato porque claro como les gustan los resultados pues bueno seguiremos adelante hoy

de derecho ese gran estado de derecho hoy vuelve a imputar a personas

ese gran estado de derecho ese gran estado de derecho que aparentemente es garante del autogobierno de este país

garraztasuna sobra goxotasuna falta garraztasuna sobra goxotasuna falta norekin paktatu

otra vez la alquimia moral características de eh bildu es alquimia moral tienen una habilidad tremenda

en virtudes y las virtudes en vicios dependiendo de quién es el sujeto activo es decir si soy yo o los de mi grupo virtud

los de los otros grupos vicio alquimistas morales una habilidad sorprendente eso ya fue

algo es mucho señor bollain algo es mucho y sí le voy a responder señor damborenea cuando usted dice es que digo que no tienen rumbo porque da igual con unos que con otros

usted dijo estos presupuestos no son ni de lejos nuestros presupuestos no son sus presupuestos y usted lo sabe y lo reconoce y lo reconoció aquí

que tienen cada uno de ustedes y cuáles son las reglas del juego político en una negociación presupuestaria y todo el que tenga algo de conocimiento

sabe cuál es el margen y que hay una limitación financiera para poder llegar a unos acuerdos y que esos acuerdos tienen un límite y usted sabe cuál es la incidencia de ese límite en el presupuesto y dice yo voy a aprovechar la oportunidad como grupo yo lo voy a aprovechar voy a poder decir que doy estabilidad que favorezco

y además voy a fortalecer algunas políticas que para mí son determinantes y algunas de ellas nosotros estamos encantados cuando apoyan medidas en empleo

que no nos gustan y ustedes se van a abstener ante un presupuesto que hay muchas partidas que no les gustan usted ha mencionado algunas de ellas

emango eutsuena aprobetxatuko bazeunkie aukera